halakoa da bizitza no sé si conocéis o recordáis la paradoja

me imagino que algo os sonará muestro un gráfico para refrescar memorias

aquiles nunca iba a alcanzar a la tortuga porque cada vez que aquiles hiciera un recorrido

y así indefinidamente esto es muy anti intuitivo y la lógica enseguida nos dice la razón por la que aquiles va a ganar la carrera porque aquiles

en un programa de deportes después de la carrera por qué aquiles ha ganado diría

he corrido bien he ido rápido pero aquiles iba más rápido y esta

cuando escuché las explicaciones de la consejera arantza tapia de la consejera de desarrollo económico sobre por qué habíamos bajado de la segunda a la tercera división europea en el ámbito de la innovación

y ella entre otras cosas respondió nos encontramos con un estudio que confirma que a día de hoy euskadi es más innovadora que hace dos años es así ha mejorado un doce por ciento de media a lo largo de los últimos años sin parar en esa mejora

otras regiones europeas han innovado más han ido más rápido han llegado a un diecisiete por ciento por tanto nuestra posición relativa ha empeorado bien aclarado la culpa no es nuestra nosotros como la tortuga vamos para delante la pena es que estos europeos

corren más que nosotros y nos han adelantado por eso el resultado es el siguiente

tercera división si la media de innovación evidentemente se sitúa en cien hemos pasado del noventa y uno al setenta y ocho tercera división europea

ha fracasado y ya sé que son palabras mayores que no se deben decir a la ligera

en la cualitativa y en la cuantitativa en la cualitativa por lo que acabamos de comentar

sino combina hasta diecisiete indicadores y a partir de ahí realiza una visión

porque en un índice como el indicador el panel europeo de innovación regional hemos perdido la categoría con un fuerte retroceso y adquiriendo una enorme

sino ante la propia media europea en innovación nos dice tres cosas muy graves nos dice primero que hemos pasado de ser

a una región de innovación moderada esto es lo que decía hemos pasado de la segunda categoría porque aunque nos vendieran la moto de que éramos lo más de lo más

a tercera categoría en el año dos mil diecisiete alcanzamos un noventa y uno coma cuatro por ciento de puntuación con respecto a la media europea y en el año dos mil dieciocho

y en el ranking de regiones europeas somos en innovación la ciento treinta y dos entre doscientos treinta y ocho cuando en el ámbito de la renta per cápita por ejemplo estamos en el ciento veinte por ciento de la media europea en el ámbito de la innovación

que tiene las condiciones y el potencial para ser puntera y además la obligación de ser puntera en el ámbito de la investigación nos estamos quedando atrás

es del estado que nos penaliza en el ranking es verdad que estar en el estado español

es de las empresas no sé ese día debía estar de vacaciones el departamento de echar las culpas a bildu y a ela porque no nos mencionan pero las empresas los europeos en fin todos menos la política del gobierno

y decía que se ha fracasado en este indicador cualitativo muy completo que es uno de los mejores referentes que podemos tener pero también en el cuantitativo badagoelako bigarren

el plan de ciencia y tecnología que es el plan estratégico rector de la política de ciencia y tecnología en el país

se iban a invertir en investigación y desarrollo

renunciaba al objetivo europeo del tres por ciento porque ni siquiera llegando a esa cantidad se hubiera alcanzado el objetivo del tres por ciento para situar a los menos conocedores del asunto que la estrategia europa dos mil veinte es decir una estrategia oficial de la unión europea recomendaba

los estados trataran de llegar al tres por ciento no era vinculante no era obligatoria la unión europea lógicamente conocía

nuestro país nuestra comunidad eligió no aspirar al tres por ciento no diseñar

los objetivos que se planteaban en el pcti no se han cumplido vamos a hacer un pequeño repaso de la evolución

en dos mil dieciocho tenemos el dato del pib definitivo pero no tenemos el dato

en el cual dice que calcula que un cuatro por ciento va a subir con esa subida del cuatro por ciento

pero seguiríamos en un ochenta y cinco si en dos mil diecinueve vuelve a subir un cuatro por ciento la inversión

estaríamos en el uno coma ochenta y ocho y en dos mil veinte el año final del pcti

son proyecciones explicado con qué método se han hecho esas proyecciones pero basadas evidentemente en los datos oficiales más recientes de los que se disponen

en el año dos mil veinte último año de vigencia del pcti es que el parte de dos mil quince y el último dato disponible en dos mil quince era dos mil catorce

lo que significa que hemos hecho un plan estratégico que vuelve a ser aquello como el parto de los montes volvemos

cinco años de plan estratégico para estar un poquito peor que al principio yo creo que esto es bastante serio la unión europea no ha bajado en el esfuerzo

era incrementar la inversión en este ámbito en quinientos ochenta y tres millónes

preveía o aspiraba a aumentar un cuarenta y cuatro por ciento la inversión

de aspirar al tres por ciento que recomendaba la unión europea pero aun así no se van a cumplir

los últimos datos y dado el corto plazo de tiempo que queda que nos demuestran que es imposible alcanzar los propios objetivos del pcti según el cálculo que hemos expuesto anteriormente

lo que supondría un quince por ciento de incremento es decir la tercera parte de lo que se aspiraba

el de la realidad virtual el de la realidad virtual que genera este gobierno a través de su ingente aparato de propaganda para tratar de convencer a las gentes de este país

en investigación y en tecnología no es verdad los datos nos demuestran que no es verdad el otro día no sé este periódico es una anécdota un periódico que me repartieron en el metro en la vanguardia energética

orientación política pueda tener este periódico sé que

un titular que como un sirimiri repite palabra vanguardia energía tecnología innovación líderes líderes los mejores alemania viene a aprender es un sirimiri que va calando en realidad es la inauguración de una electrolinera que es más un experimento porque primero no hay coches eléctricos

porque ningún coche eléctrico en el mercado puede cargar a esa potencia pero lo importante no es eso lo importante es el sirimiri que entremos al metro con un periódico que nos dice

no es ni de izquierdas ni de derechas porque normalmente cuando se dice eso viene algo que es muy de derechas

vasco o medio pensionista todos queremos que las salidas de emergencia funcionen y en este caso la tecnología no es neutral la investigación no es neutral el modelo productivo no es neutral puede tener unas connotaciones o se puede desarrollar en un dirección o en otra eso es evidente

el gobierno de corea el gobierno de alemania el de suecia y el de estados unidos en lo que todos están de acuerdos los gobiernos y en los partidos políticos responsables

es reforzar y multiplicar las inversiones en tecnología porque solo así hay una garantía de futuro este no es un acuerdo contra el gobierno esto no es un acuerdo

es un acuerdo para dar a esta comunidad un objetivo compartido en un sector estratégico que nos pueda permitir afrontar el futuro con unas mayores expectativas de solidez económica para poder generar y repartir más riqueza entre nuestra gente pilota

este tema porque además supone una fuente de empleo cada vez más importante pero que tiene que crecer en cantidad y en calidad el eustat

en euskadi en este sector pero no es suficiente

horizonte mayor en cantidad y en calidad no voy a repetir los datos que ya se han dicho que tenía muchos de ellos pero

europeo yo creo que es muy preocupante la situación de euskadi en ese

de esos grandes titulares que tenemos en euskadi en los medios de comunicación sobre la innovación

muy positivas pero el índice yo creo que es muy clarificador también de dónde nos sitúa pero también tenemos que llamar la atención sobre las condiciones laborales también en el sector de la investigación porque no son las deseadas y la precariedad reina en este sector en la carrera investigadora en la universidad por ejemplo

es verdad que en la administración y es verdad que en la universidad el índice de mujeres investigadoras es

seguramente se me diga que el gobierno poco tiene que hacer con las condiciones laborales y con la presencia de mujeres u hombres en la carrera investigadora pero yo creo que si

privadas y ahí están el dinero público tendríamos que ser responsables con las condiciones laborales con las que se ejecutan esas en investigación y también con el no fomento que se está haciendo ahora de la contratación de mujeres investigadoras por ejemplo y creo que ahí tenemos mucho por hacer esa diferencia de

urrun es verdad que en dos mil diecisiete subió unas décimas y que probablemente en dos mil dieciocho cuando estén los datos finales también hayan subido unas décimas pero estamos

señor casanova de aquiles y la tortuga pero estamos muy muy muy lejos

hay que llamar la atención sobre quien ejecuta

las empresas un setenta y cinco por ciento pero hay un veinticinco por ciento algo más que lo ejecuta la administración que lo ejecutan

más allá de las empresas que creo que es tarea de este gobierno el reforzar la inversión en el sector

y en las propios centros públicos de investigación porque esa financiación

son datos que nos estamos liando pero estamos diciendo que ese cuarenta por ciento de inversión pública

hay un gran margen de mejora para que los centros públicos se refuercen que yo creo que tiene que ser la acción principal de un gobierno que los centros públicos de investigación se prioricen que se priorice la generación de patentes públicas que se generalice

venta de productos a través de las patentes públicas con el objetivo de financiar también más proyectos de investigación y con un objetivo claro que es mejorar el bienestar de la ciudadanía porque yo creo que el comentario que ha hecho el señor casanova yo creo que es muy impertinente es verdad que esto

creo que sí que también es un debate ideológico porque la investigación para nada es neutral sobre todo partiendo de quién lo hace y para qué lo hace por eso también hacíamos nuestra

egongo dira pero creemos creemos que debería de haber mimbres en esta cámara entre los distintos grupos parlamentarios serio incluso sosegado si hoy no es día que parece

de acuerdo pero creo que hay que ir construyendo en todas las partes un gran pacto

de lo que queremos que sea la economía y la sociedad vasca creo que merece la pena poner las bases de la sociedad del mañana entre la mayoría de los agentes

en ese diseño y creo que hay que adoptar compromisos serios y cuantificables hasta ese tres por ciento porque

en la enmienda conjunta del pnv y el psoe en dos mil diecisiete ya les decíamos en los presupuestos

pero con ese objetivo no vamos a llegar al objetivo del tres por ciento con ese compromiso perdón del cinco por ciento no vamos a llegar a ese objetivo hasta dentro de dieciséis o diecisiete años vamos a llegar tarde o vamos a llegar pronto a la carrera por la investigación y por el desarrollo

pequeño pero como no adoptemos en estos momentos las bases y adoptemos las decisiones presupuestarias adecuadas no vamos a ser capaces de diseñar un sistema económico y social que funcione

plazo creo que hace falta menos palabras más hechos y sobre todo más presupuesto eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

son indicadores claves es el potencial de desarrollo económico de un país son condicionantes de su productividad

un factor determinante para lograr un crecimiento sostenible la implicación de los socialistas vascos por el impulso de la investigación del desarrollo y de la innovación ya viene de lejos

la noticia destacada en los medios de comunicación era que el gasto

frente al dos coma siete por ciento de la unión europea y frente al uno coma tres por ciento

la inversión en esta materia había crecido a un ritmo tres veces superior a la media de la unión europea y también casi había triplicado la de españa la inversión

al dos coma doce por ciento en el año dos mil doce cuando la media de los países de la unión europea era del uno coma noventa y uno por ciento en dos mil ocho

impulsó la investigación y el desarrollo como una política anticíclica a implantar sin ambages porque teníamos claro que el futuro de la economía vasca

y tenemos claro también que euskadi solo es y será competitiva a escala global si parte del conocimiento en que se basa la competitividad

presentamos como ya se ha dicho aquí en el año dos mil quince siendo oposición entonces una iniciativa relativa a impulsar el pacto por la investigación un pacto que se aprobó en esta cámara

la pusimos en práctica y la hicimos realidad los socialistas vascos con el gobierno de los nacionalistas vascos los presupuestos para euskadi del año dos mil dieciséis que incluían ese incremento presupuestario del cinco por ciento en los fondos destinados a investigación científica y meses más tarde en abril del año dos mil dieciséis

euskal herria bildu propuso una iniciativa sobre la política desarrollada por el gobierno en relación con la situación creada por la grave crisis que sufría

y las perspectivas de futuro de aquel debate resultó el acuerdo que hoy nos transcribe

elkarrekin podemos esta iniciativa se registró en diciembre del año dos mil dieciséis el debate plenario de la misma se pospuso en mayo del dos mil dieciocho y hoy finalmente tres años después de registrarse aquella iniciativa hoy llegamos a su debate

esta iniciativa yo creo que tiene tres aspectos a debatir el objetivo del tres por ciento la fecha de llegar a ese tres por ciento y la estrategia a aplicar y hoy estamos

una legislatura que además tiene características diferentes políticas además diferentes a las de hace dos legislaturas una legislatura además con un gobierno de coalición con un acuerdo de gobierno partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra que propone sobre este asunto

desarrollando la estrategia de especialización inteligente ris tres euskadi con el compromiso de un crecimiento anual del cinco por ciento del presupuesto público durante al menos un ciclo

para estimular la inversión público privada en este ámbito y reforzar la posición de euskadi como región europea innovadora

de evolucionar hacia el tres por ciento de inversión público privada

porque supone implementar en las cuentas presupuestarias para el año dos mil veinte además de los cuatrocientos setenta y cinco millónes de euros de compromiso del pacto por la investigación supone añadirle

hoy el compromiso podría estar más cerca de llegar al dos por ciento y evolucionar hacia un tres por ciento no sin riesgos por supuesto la economía no está para muchas alegrías todos somos conscientes de la última

con lo cual no dejaría de tener riesgos pero siendo realistas

no va a encontrarse con el objetivo del tres por ciento y esto no lo décimos ahora ya se venía diciendo en los planes de evaluación del plan de ciencia tecnología e innovación

en la primera evaluación que se realizó en el año dos mil diecisiete pero el esfuerzo del gobierno

además el gobierno plantea desarrollar cien proyectos estratégicos de investigación

de investigación se plantea también el compromiso de promover un plan especial de recuperación incorporación y consolidación de talento científico en colaboración con las empresas las universidades y los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología en el que además de cuantificarse los objetivos para incorporar jóvenes investigadores al tejido productivo vasco

y para los socialistas vascos la generación y la adquisición de conocimiento

principal motor de competitividad de las empresas por eso hay que apostar por la investigación por eso hay que apostar por el desarrollo tecnológico y por la innovación como una estrategia a corto

ustedes la necesidad de una estrategia esta estrategia ya existe nos podrá gustar más o gustar menos porque no alcanzamos el objetivo del tres por ciento pero es una estrategia que va encaminada a esa evolución hacia el tres por ciento y a conseguir los máximos entre los quince planes estratégicos comprometidos por el gobierno vasco para esta legislatura contamos con ese plan de ciencia tecnología e innovación

contamos con una estrategia de especialización inteligente para potenciar el desarrollo económico y sostenible del país vasco y este plan va a ser monitorizado y evaluado anualmente otro de los elementos importantes de la iniciativa era la fecha que se fijaba para este objetivo ahora la han puesto para el dos mil veintitrés me parece con los informes de evaluación

en esa fecha podríamos estar si todo fuera bien a nivel económico superando el dos por ciento y evolucionando hacia el tres por ciento aunque efectivamente la desaceleración de la economía no es precisamente

ni tampoco para europa para que siga progresando en ese porcentaje de investigación y para cumplir el escenario económico que se marca en el plan de ciencia y tecnología

de apalancar los fondos privados a través de los programas de ayudas a la investigación empresarial en noviembre del dos mil dieciocho en los medios de comunicación se producían titulares

consolidaba un cambio de tendencia después de tres ejercicios negativos estamos hablando

de las que el treinta y cinco coma ocho por ciento son mujeres en cuanto a la financiación

a través de empresas y el crecimiento de la financiación pública

cuatrocientos cincuenta y siete millónes de euros un treinta y tres coma seis por ciento del total de la financiación en febrero de dos mil diecinueve respecto a la investigación internacional

un hueco en el ámbito de la investigación internacional hasta convertirse en un referente europeo y se decía que la investigación en euskadi atrae dos euros por cada euro que se invierte por tanto se hace más necesario que nunca seguir comprometidos con el acuerdo de gobierno para incrementar ese cinco por ciento porcentual

aprovechar la capacidad incentivadora de generar la adicionalidad que los fondos públicos han demostrado tener sobre los fondos privados en materia de investigación y de innovación y esto implica un esfuerzo presupuestario muy por encima del crecimiento esperado de la economía vasca que conllevará la asignación de mil setecientos setenta y tres millónes de euros a programas de apoyo

durante la actual legislatura frente a los mil seiscientos treinta y nueve millónes de euros que preveían inicialmente en los escenarios económicos del pcti bi mila hogei concluyendo

la realidad económica y presupuestaria no nos permite comprometernos a lograr ese objetivo

sí existe un claro compromiso del gobierno por mantener ese incremento presupuestario

para incrementar nuestro gasto en esa materia y evolucionar hacia el tres por ciento

la captación de financiación privada sobre todo de los agentes cuya investigación está más cercana al mercado y respecto al asunto de que este no se trata de un acuerdo

pretendieron ustedes al menos hablar con el partido socialista ni ahora han pretendido llegar a ningún acuerdo con el partido socialista de euskadi nada más y muchas gracias

que todavía recuerdo tengo en la memoria y al ver el orden del día de hoy

lo primero que vino a mi cabeza fue una de esas canciones por llamarle de alguna manera que empezaba diciendo buscando en el baúl de los recuerdos se acuerda

la firmó usted el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis exactamente el mismo día que el lehendakari urkullu tomaba posesión en gernika del cargo para la legislatura actual

para que el tema se debatiera en esta cámara todavía no había gobierno y usted ya se movía nervioso por este asunto denok espero genuen gai hori berehala sartuko zela

en el orden del día para el pleno del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho un año y medio después e imaginé

y que usted preocupado apelaba a debatir sobre el tema hasta que el día treinta de mayo un día antes solicitó la posposición del debate

todo volvía a estar en su sitio si usted no llevaba el tema al pleno

mi sorpresa es su rescate de aquella reliquia para sustanciarla hoy que han transcurrido solo dos años diez meses y diez días exactamente

dónde ha quedado aquella urgencia inicial como si le fuera la vida en el asunto

que no era tan urgente o que la oportunidad de sacarla no la encontraban en su recorrido por esta legislatura que siempre había cosas más urgentes y eso me lleva a la reflexión de si ese sorpresivo rescate del baúl de los recuerdos es porque cree que puede ser que es la oportunidad de presentarla

que ya no tienen otros asuntos que debatir que se les ha agotado la mercancía opositora y que esto es una especie de resto de serie ahora bien

que es una mímesis de la moción presentada en abril del dos mil dieciséis en la que solicitaban al gobierno ya se ha dicho aquí

ya se les dijo como les voy a decir hoy que ya existía una estrategia el pcti dos mil veinte

en marcha precisamente hasta el año que viene también es cierto que la legislatura finalizó en julio del dos mil dieciséis

no es que el gobierno no la hizo es que si hubiera empezado a hacerla no tenía tiempo para hacerla

aunque las personas parezcan las mismas incluso lo sean el parlamento es otro es nuevo y el gobierno es nuevo es otro eso sí

anteriores propuestas las hace de nuevo otra cosa es cuánto tarde en sustanciarlas

y según la evaluación disponible el grado de cumplimiento de las inversiones previstas en el pcti del dos mil catorce al dos mil dieciocho alcanzó el noventa por ciento seis mil seiscientos cuarenta y dos millónes de euros frente a los previstos siete mil trescientos cuarenta y nueve y todavía queda un año

con crecimientos anuales esta legislatura del cinco por ciento las empresas con un ochenta y cinco por ciento y la financiación internacional con un ciento dos por ciento

la planificación prevista en el dos mil catorce al menos en lo que respecta a la financiación pública que es la que le corresponde al gobierno vasco que es lo que se controla desde este parlamento se está cumpliendo con creces pero usted no analiza el hecho simplemente vuelve a pedir básicamente que se diseñe una estrategia en la que lo único que tiene claro es que la inversión tiene que llegar al tres por ciento

por qué exactamente el tres y no el dos el cuatro salvo que es la cifra que la

auto impuso se auto sugirió cuando hoy entre los países de la ue veintiocho solo hay cuatro que superan el tres por ciento creo que son suecia alemania austria y dinamarca hay cinco que están entre el dos y el tres

españa en el uno coma dos y la ue veintiocho justo en el dos es decir la propia ue veintiocho ha incumplido su compromiso inicial

que no podemos olvidar a pesar de todo estamos más o menos en la mitad

también se lo voy a decir aunque usted lo sabe con los escenarios económicos del pcti euskadi

acercarnos aunque es un reto con riesgos porque implica

esa tasa fue negativa en el dos mil dieciséis ligeramente positiva y en el dos mil diecisiete ha subido un tres coma seis por ciento

y además usted es muy concreto en la cifra de crecimiento el tres por ciento

en los incrementos de las aportaciones de los diferentes agentes del sistema no sé si porque no lo sabe o no lo quiere decir solo sugiere más o menos que la gente hable y se reúna

y objetivos que la sola inversión por eso el pcti contempla objetivos como definir prioridades

fortalecer el tejido industrial elevar la excelencia del sistema vasco de ciencia

y el desarrollo todas estas que he citado son solo algunas de las líneas estratégicas y objetivos del pcti independientemente del compromiso de ir incrementando paulatinamente el presupuesto público

presupuestarios se deberá preocupar el resto de agentes todas estas líneas

y se reproche al gobierno que no alcance algunos de los objetivos que se había propuesto pero que lo reduzca todo a millónes de euros

pues me parece una simplificación excesiva en este país parece que todo se resuelve con presupuestos nadie habla de ideas

de trabajar para y usted además se ciñe inicialmente a que esa cifra se alcance en dos mil veinte ahora nos ha dado tres años de oxígeno que bueno pero en cualquier caso ese incremento es para ya mire y si el sistema no tiene los suficientes científicos y técnicos para absorber esa cantidad ingente de presupuesto que hay que añadirle al sistema y si las empresas no pueden poner más presupuesto del que pones qué hacemos con ese tres por ciento del pib en grandes números y lo voy a explicar muy sencillo el pib

el tres por ciento es dos mil cuatrocientos millónes de euros la proyección

de los cuales el gobierno va a poner cuatrocientos ochenta las empresas ochocientos cuarenta y centros tecnológicos y captación de fondos internacionales unos doscientos veinte básicamente esto supondría

no van a cambiar sustancialmente que no parece al menos en el corto plazo supondría que para alcanzar esa cifra ayudada por ustedes el gobierno debe de hacer un esfuerzo supletorio para el año que viene para el veintitrés

me puede sugerir de qué partida recortamos para llegar a ese añorado tres por ciento

más cuando venimos de una crisis económica que nos obligó a determinadas desaceleraciones para priorizar las capacidades sociales del presupuesto

toca seguir creciendo pero con realismo con posibilismo sin poner en riesgo otras políticas e incrementando un presupuesto de un modo compartido

y con capacidad de ir sumando recursos humanos a la innovación de un modo que sea

dos cosas para terminar no siga dando tantos datos porque se lía porque

de renta per cápita cualquier lógico simplista sacaría unas conclusiones que no serían buenas ni para usted ni para mí

que están deteriorados y no hay más que mirar la enmienda incluso la enmienda transaccional que ustedes han presentado muchas gracias eskerrik asko tellería

muchas gracias señora presidenta es una pena que este debate lo tengamos que tener

que como fue en su momento hace dos años no hicimos enmiendas pues tampoco hemos podido enmendarla ahora porque es evidente que hubiéramos hecho una enmienda

prácticamente casi todo lo que ha dicho el señor casanova la política

ha fracasado en el cualitativo es evidente que el pacto al que llegamos todos los grupos de esta cámara

digo todos en el dieciséis que venía del acuerdo del quince que el pnv no estaba pero se sumó en el dieciséis es evidente que ese acuerdo

de hecho el señor casanova en la transacción que hace le da una patada de tres años donde ponía dos mil veinte pone dos mil veintitrés porque es evidente que ya es inviable e imposible rescatar ese acuerdo y ese pacto

de que el gobierno del señor lópez elevó el porcentaje

pero no porque fuera un entusiasta sino porque en los presupuestos que nosotros le fijábamos lo hicimos así

ahora dese usted cuenta que los socialistas han vuelto al gobierno y llevan tres años

y estamos por debajo de esa cifra y el tema es cuantitativo pero también es cualitativo nosotros llevamos años pidiendo oiga porque aunque sea

dedicamos un pastón y nosotros hace años que llevamos pidiendo en el cualitativo ese que alguien ha hablado hoy es oiga esto en qué se traduce en qué patentes se traduce qué está aportando de verdad al tejido industrial y económico de este país cosa que a día de hoy

y por qué nos hemos abstenido y nos vamos a abstener a todo lo que se ha planteado a lo primero porque es inviable es decir o sea el acuerdo que es la repetición de lo que nos trae bildu de hace tres años

porque se ha incumplido de tal forma que ya no es viable lo que hace tres años se planteaba como viable por todos los grupos de esta cámara incluido el partido nacionalista vasco de que en el dos mil veinte

ahora ya todo el mundo dice que es imposible de hecho la enmienda del psoe y del gobierno ni siquiera dice

dicen evolucionar hacia eso es lo que dice la enmienda

ni siquiera el objetivo que todos por unanimidad fijamos hace tres años lo contempla ya este gobierno

por tanto señor hernández el pacto que evidentemente llegamos hace tres años pues hoy no existe porque es que se ha incumplido o sea vamos a ver no se ha hecho nada de lo que teóricamente se tenía que haber hecho

que haber planteado y por eso nosotros lamentamos que el debate este hoy lo tengamos sobre una iniciativa de hace dos años que ya no da margen y que hace dos años podía tener su interés en decir que se cumpla

o pasar del veinte al veintiuno o veintidós pero hoy nosotros entendemos que ese acuerdo ya no da más de sí

me he molestado en ver la ejecución de este año del gobierno vasco

es aburrido lleva bastante tiempo y vamos viendo lo que ocurre en cada departamento porque en todos los departamentos hay partidas

incluida lehendakaritza fondo de innovación programa cinco mil cuatrocientos catorce

a treinta de septiembre obligaciones reconocidas

promoción talento atracción investigadores internacionales ikerbasque obligaciones reconocidas cero más de dos millónes de euros esta es la ejecución de este año a treinta y uno de septiembre con los datos del gobierno vasco

si me voy a departamento de desarrollo económico que lamento que no esté la señora consejera

me voy a investigación y desarrollo programa cinco mil cuatrocientos once a otras empresas programas de ayuda a la investigación

obligaciones reconocidas noventa y nueve mil no sé qué porcentaje es no llega ni al cinco por ciento no si vamos al de tecnología

presupuesto ciento sesenta y ocho millónes de euros obligaciones reconocidas treinta y nueve treinta y nueve millónes esto es lo que está ejecutando este año el gobierno vasco si me voy a la dirección de energía y minas que tiene tecnología y fondo para innovación trescientos veinticinco mil euros

si sigo con el fondo de innovación ciberseguridad spri transferencias de capital cero

si me voy al programa de desarrollo industrial y apoyo a emprendedores

transferencia a fomento del emprendimiento ayudas a emprendedores cuatro millónes

disposición de gasto cero obligaciones reconocidas cero pagos cero treinta y uno de septiembre de este año

al departamento de medio ambiente porque aquí hay para todos me voy al programa

lo han rebajado el presupuesto prorrogado de uno coma cinco millón a novecientos cincuenta mil ejecución cero

en blanco señor consejero sí me voy a educación

innovación de centros fp y pymes programa cinco mil cuatrocientos catorce bi milioi hirurehun eta laurogei mila cero

de este gobierno en educación programa apoyo a investigación a la excelencia oiga dos millónes cien mil cero

salud porque todos los departamentos colaboran aquí en esta superejecución verdad proyectos de investigación sanitarias dos mil diecisiete dieciséis agencias de evaluación programa cuatrocientos catorce investigación y planificación sanitaria un millón trescientos mil disposición de gasto

cero y el resto de salud el fondo de innovación

en blanco estos son los datos que el gobierno nos ha mandado el otro día y que disponemos todos los parlamentarios de la ejecución del presupuesto de este año en materia de innovación

ha fracasado que no es una prioridad

yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los representantes del partido nacionalista vasco y del partido socialista de que ya no es viable porque es verdad lo han convertido en inviable

no vamos a aprobar lo que ya aprobamos hace tres años señor casanova porque ha demostrado que esto ha fracasado es decir que es inviable y lo que hay que hacer es plantearse otras cosas

el gobierno se tiene que plantear los incentivos que les damos a las empresas

también es un fracaso usted me hablaba antes de la crisis económica pero bueno esa crisis económica

vascas que son digamos en las que más ha repercutido la caída

y ahora los datos que tiene también usted de octubre

que las empresas no están yendo muy bien si la recaudación baja tienen menos beneficios pues evidentemente van a tener más dificultades para aportar

y todo esto ha ocurrido aprovechando que esta el señor consejero de hacienda con un dos mil diecisiete

y con un dos mil dieciocho con un superávit presupuestario de más de quinientos millónes de euros de más de quinientos millónes de euros

que en los seis primeros meses teníamos un superávit de más de doscientos cincuenta millónes de euros y sin embargo claro tenemos superávit porque luego en la ejecución

pero nosotros estuvimos en aquel pacto con el señor lópez amaitzen

y la investigación fuera para adelante a pesar de la crisis económica del dos mil nueve

porque nosotros hemos estado siempre en todos ellos ahora bien nosotros lo que entendemos es que este debate hay que empezarlo de cero

sobre unas bases nuevas porque es evidente que las que tenemos y tal como lo tenemos no está funcionando eskerrik asko damborenea jauna

bueno ya me quedo más tranquilo entonces según el partido socialista y el partido nacionalista vasco

en el año dos mil veinte llegaremos al dos por ciento o nos acercaremos de inversión

a dos mil diez eso que es regreso al pasado usted que habla tanto de reliquias el objetivo es estar en los datos del dos mil diez pues vaya

sabe lo que es una cifra inventada y sin ningún sentido decir que la apuesta estratégica de

porque se lo han inventado simplemente para poder decir que cumplen sus objetivos

que no es referente en ningún marco internacional que no se pude comparar con nada para decir que cumplen

cuando se topan con un objetivo difícil entonces ya empiezan

yo he invertido mis quince minutos en tratar de mejorar la política

usted ha gastado su tiempo en generar humo y no entrar al fondo de la cuestión esa es la diferencia entre gasto e inversión lo que es una reliquia en estos momentos es un pcti obsoleto y que ha fracasado en todos sus objetivos y usted me viene a decir que no hace falta una estrategia porque ya no hay una estrategia y que puede que no le guste que no es que me guste o me deje de gustar me decía la señora que no es que me guste o me deje de gustar

yo lo que quiero es que una estrategia funciones y se evalúe en función de una serie de indicadores objetivos para medir sus resultados y yo lo que estoy planteando aquí

tengo una economía que está en el ochenta por ciento del nivel de innovación de la unión europea y está en el uno coma ochenta y cinco de inversión

eso son los datos eso es un éxito eso es decir que ya tenemos una estrategia

por qué para el partido socialista en el año dos mil dieciséis alcanzar el tres por ciento era un objetivo

pues todos sabemos evidentemente lo que ha cambiado que ahora están ustedes en el gobierno y no les quieren incomodar por eso no hablé con ustedes hablé con el responsable de este ámbito con

a romper la disciplina de gobierno y a retomar el acuerdo del dos mil dieciséis y en vez de un tres me pone un dos coma ocho si quiere hablar de más realismo si quiere hablar de plazos

igual que al partido porque ustedes tienen la costumbre de que cuando un tema

el partido que gestiona esa consejería se encarga de la negociación y el partido que gestiona esta consejería me dijo bien claro na nai na nai porque están muy contentos porque están muy contentos porque les va bien en términos electorales porque han conseguido generar esa realidad virtual datos uno coma ochenta y cinco datos

la inversión en cinco años aspiran ustedes a que estemos igual que en dos mil diez esta es la relación entre la tasa

y el desempleo y este es el mapa de europa aquí vemos alemania suecia cuanto más alto y a la izquierda es lo lógico cuanto más

una economía y nosotros estamos en el ciento veinte por ciento de la media europea porque tenemos una potente inercia industrial porque aquí ha habido un tejido industrial fortísimo

y solo nos va a permitir seguir en ese ciento veinte por ciento o a aspirar a más si se hace una ingente inversión en modernizar actualizar y hacerlo más eficiente en el concurso internacional porque somos una economía industrial y exportadora y solo podemos seguir fabricando productos industriales y seguir exportándolos si invertimos

tenemos muchas propuestas pero aquí no veníamos a proponer un plan veníamos a proponer una metodología una metodología que consistía en marcar un objetivo y establecer un proceso de gobernanza

una interlocución con los agentes sociales y luego un debate parlamentario

le voy a dar una no malvender las empresas tecnológicas punteras de este país que pertenecen en parte al gobierno como euskaltel eso sería un consejo dar una estabilidad presupuestaria a la universidad para que no tenga que depender de los presupuestos cada año eso es otra tratar de atraer investigadores

esa sería otra atraer a las mujeres a la industria y a la tecnología crear dice usted es que no sabemos si va haber suficientes profesionales para responder a ese aumento de la inversión llevan años en el gobierno no saben y tienen capacidad de hacer una prospectiva de qué áreas se van a necesitar en el futuro e inducir e

a que efectivamente estudie y desarrolle su carrera profesional en esos ámbitos que se van a necesitar pues ahí tiene

las relaciones con los dos principales sindicatos de este país y así podríamos seguir pero el objetivo de hoy no era establecer

el plan ha fracasado en términos mensurables objetivos ochenta por ciento en innovación con respecto a la media europea un ochenta y cinco aspiraciones máximas que nos proponen

un impulso y nosotros veníamos a proponer ese impulso no se nos había olvidado que esta era la primera iniciativa que planteamos en esta legislatura no se nos había olvidado en absoluto

está igual de vigente que en dos mil dieciséis cuando la presentamos sería una reliquia

moción la misma propuesta que hace tres años presentamos y tiene exactamente el mismo vigor porque no se han conseguido ninguno de los objetivos y porque sigue siendo necesario

proponíamos y seguimos proponiendo y lo volveremos a intentar una reforma de las políticas una reforma consensuada una reforma

porque el tres por ciento al menos como objetivo es irrenunciable ustedes se instalan en el conformismo y les preocupa mucho más convencer a la gente de que somos una potencia tecnológica que realmente

que constatar algo de este debate es que hay gente en esta cámara que no ha querido debatir el señor

del señor casanova podría ser nuestra podría ser del partido popular y yo creo que

y se sentara ahí arriba y le estuviéramos contando que estamos hablando de innovación y desarrollo y vieran

pediría disculpas a parlamentarios hablar de que si usted registró una iniciativa no sé qué día el otro día no sé cuál el otro día me trajo una

sobre un tema que estamos hablando de innovación a ver de cuándo es cuándo deja de ser

la presentación de la iniciativa yo creo que sería como para que nos

nos fuéramos a nuestra casa creo que eso es bastante ilustrativo de la calidad

del pasado ha hablado de nuevo del gran ausente de esta cámara que es

porque menos mal que estuvo ese gobierno y es cierto y es cierto que ese dato está ahí pero es que ustedes ahora están renunciando incluso a llegar a la cifra con la que salieron del gobierno ya lo ha explicado también el señor

el debate igual nos podemos hasta poner de acuerdo para organizar el debate entre todos y hacer un acuerdo en esta cámara que no será solo en esta cámara porque también

la formación profesional y los centros públicos de innovación por nuestra parte

ese debate cuando entre todos y todas queramos pero estábamos hablando de esta iniciativa en concreto y las propuestas que se ponían se volvía a revisar ese plazo que desde dos mil dieciséis no se ha cumplido y la excusa es como no se ha cumplido

no llegamos y encima están los datos de inejecución que yo creo que más que de ejecución serían de inejecución que ha dado el señor creo que alejan todavía más de cualquier acercamiento

pensar un poco de la verdadera política de humo que se está haciendo con los planes de innovación y a mí me gustaría felicitar ayer tuve una reunión con el viceconsejero de formación profesional estuvimos hablando de proyectos muy concretos que son exitosos y que incluso

y apoyar en eso no tengo ningún problema y hay proyectos el señor

visión catastrofista de este asunto pero que estamos lejos de ese tres por ciento yo creo que es una realidad más que evidente si

el dato yo creo que es como para que nos lo hagamos pensar si seguimos inyectando

que esa es otra ese cinco por ciento anual son dieciséis o diecisiete años para llegar a esa recomendación de la unión europea que podríamos decir vamos a analizar las condiciones

a un acuerdo entre todo el mundo no creo que tampoco haya que hacer

en ese sentido son dieciséis o diecisiete años y se han puesto ejemplos aquí de la velocidad que están cogiendo determinados países y determinadas regiones en política de innovación

de la comparativa regional europea de ciento treinta y dos de más de doscientos regiones nos sitúa bastante a la cola estaremos a la cabeza de regiones del estado español pero estamos por debajo de la media de las regiones de la unión europea por lo tanto yo creo que si estamos todos dispuestos podemos llegar a hacer un acuerdo en ese sentido

que decía el señor tellería estamos hablando del futuro de euskadi del futuro de la sociedad del futuro del empleo y de un empleo digno para los jóvenes

los investigadores vascos y ese problema de que igual no tenemos ni siquiera tantos investigadores vamos a mirar un poquito cuántos investigadores tenemos por el mundo

vascas porque aquí no han encontrado tampoco un empleo vamos a hacer una prospección de eso

a trabajar con ganas en su país y aportar y devolver lo que a través

de la economía y del desarrollo de la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

en la oposición la propuesta a la que hacía alusión la iniciativa de bildu nosotros ya decíamos que aquel debate lo que nos daba era una oportunidad para reflexionar sobre la crisis que afectaba

porque de eso se trataba no estábamos hablando de investigación y desarrollo ese era el título de la iniciativa

yo creo que tenemos claro que la investigación y el desarrollo aplicado son fundamentales para el desarrollo de un país y si tenemos en cuenta el informe sobre evaluación de los escenarios económicos de ese plan de ciencia y tecnología e innovación euskadi dos mil veinte el objetivo del tres por ciento de las inversiones

de los cuales las empresas tendrían que contribuir con ochocientos ochenta millónes

dos mil veinte principalmente y las fuentes públicas de financiación las diputaciones forales y la administración general del estado

eso suponiendo que creciera un cinco por ciento anual y en ese escenario el gobierno vasco tendría que contribuir con mil doscientos veinte millónes de euros

el compromiso que tenemos ya de los cuatrocientos setenta y cinco millónes para dos mil veinte habría que añadir otros setecientos veinticinco millónes de euros esa cantidad no es asumible por el gobierno vasco teniendo claro que recortar la inversión

el compromiso de este gobierno de incrementar el presupuesto anualmente

público privada en investigación y desarrollo es lo que refuerza esa posición de euskadi ese compromiso de euskadi como un territorio europeo innovador

es un objetivo del que no renegamos y del que no dejamos de percibir pero hay que evolucionar ya se lo he dicho antes no llegamos al tres por ciento

empresarial yo no he oído aquí a nadie hablar del tema de la financiación empresarial y me parece que es el elemento clave e importante en este asunto así que

el movimiento se demuestra andando y en este caso el compromiso del gobierno está establecido y se ha ido cumpliendo incluso y a pesar de una prórroga presupuestaria y digo esto

digo esto porque la prórroga presupuestaria evitaba evitaba el poder invertir en el año dos mil diecinueve

de euros un seis coma cincuenta y uno por ciento más

ese es gracias a su negociación presupuestaria señores y señoras de euskal herria bildu que no pusieron en la negociación presupuestaria

ni un solo céntimo en la negociación presupuestaria esta es aunque sea un folio más pequeño esta es la realidad también de no aprobar

para sacar adelante unos presupuestos y le digo más

el partido popular ha estado jugando a hacerse trampas en el solitario

qué supone en la ejecución presupuestaria tener gasto dispuesto y gasto con obligaciones reconocidas y usted ha hecho también trampas al solitario señor damborenea

que ya está contemplada decía usted que el gobierno socialista solo no había hecho ese amago

ustedes apoyaban desde fuera con un acuerdo de bases pero usted no le dice esto a isabel celaá de que realmente no metieron en presupuestos la cantidad necesaria en el gobierno socialista y en los presupuestos socialistas para sacar adelante este porcentaje de investigación no dirá que es por usted porque es que claro

hablando de esta historia dicen ustedes dicen ustedes señores y señoras de bildu

en llegar a un acuerdo no es verdad ustedes cuando les interesa llegar a un acuerdo llaman a los dos socios de gobierno llaman a los dos en temas de relaciones laborales no se me limite usted a que como llevaba este tema el departamento nacionalista pues entonces habla usted con el pnv no

las cosas de verdad adelante ahora hay un gobierno de coalición pero no es un gobierno de coalición en el que no hablamos los socialistas porque nos incomoda nosotros no nos incomoda nada hablar de nada nos incomoda y por otro lado

oiga a un año vista de un cierre de legislatura propone una metodología esto es igual que en abril del dos mil dieciséis para luego traer en el año dos mil veinte de nuevo otra iniciativa que no lleve a nada estamos siempre un poco sobreponiéndonos a cosas que no tienen realmente ningún sentido ustedes yo lo único que les pediría sería que no sientan vértigo en aprobar unos presupuestos si realmente están convencidos de su iniciativa

y miren a ver si son capaces en esa negociación presupuestaria de llegar a conseguir ese objetivo del tres por ciento no den la puerta cerrada de salida inténtenlo

que no la investigación porque no toca así que en fin un poquito más de ser comedidos con uno mismo

arratsalde on berriro nunca nunca y he salido veces aquí en términos de la administración me ha llamado usted casanova capítulo segundo y usted se ha autollamado capítulo sexto yo soy gasto y usted es inversión

si hay una cosa el gasto siempre va a la económica real la inversión

y tampoco jamás me ha dicho nadie a qué tengo que dedicar el tiempo cuando bajo aquí por cierto

ahora si empezamos en eso a partir de ahora va a haber aquí leña

la posición del grupo nacionalista vasco hoy en el tema es suficiente aquí se viene a dejar fijo debatir las cosas con diez minutos no se pueden debatir señor martínez no se pueden debatir y usted señor damborenea claro que la ejecución que usted lee no es la correcta

eso será a final de año el año pasado cuatrocientos treinta y tres millónes

esa es la realidad de la ejecución pero vayamos al debate vamos a aclarar el debate de las cosas

estamos en un pcti que ya es un pacto es un pacto

pactando gobierno diputaciones empresas universidades

externos que evaluarán el programa y contrastarán el conjunto de la sociedad vasca podrá decir y el parlamento vasco terminará por aprobar al finales de este año creo que se va a presentar ya el primer borrador que por cierto

y contendrá todas las líneas de los ods dos mil treinta que usted

ni los ha citado lo que usted pedía volvamos al incremento

no me vaya y seguir incrementando el cambio climático con tanto gasto en papel

un incremento del treinta y dos por ciento eso es lo que se está haciendo en total

un ciento siete por ciento de la inversión inicialmente prevista inversión no gasto estos son

el gobierno quiere seguir cumpliendo su compromiso con realismo y sin las demagogias que hoy he escuchado aquí por eso incrementar un cinco por ciento esta última legislatura y se está cumpliendo porque lo que vamos buscando es un horizonte de estabilidad para empresas centros e investigadores ustedes sacan inventan el pacto social como un conejo que sale de la chistera y que euskadi debe invertir el tres por ciento ya

si estamos hablando de ciencia y nos estamos dirigiendo a investigadores mire usted aprendamos de ellos y seamos por lo menos rigurosos en los números que ellos utilizan y

y de restar porque es razonable un incremento en tan poco tiempo es eficaz en resultados científicos porque esto no es una churrería usted va a una churrería da un euro y le dan seis churros

en investigación no es así en investigación esto no funciona a golpe de talonario no se consiguen más patentes no se consiguen más investigadores formados más talento inmediatamente no se consiguen

estrategia constante continua en el tiempo y pausada con seguridad y estabilidad presupuestaria de eso se trata

una velocidad adicional y estamos dispuestos a hablar con ustedes para meterle una

pero con compromiso con constancia y con estabilidad el lema en este tema tiene que ser pan para hoy

tanto pedir tanto pedir esta legislatura se han presentado bastante presupuestos en este parlamento y si ustedes ninguno me ha dicho

no me da el tiempo y porque luego el señor martínez diría que he perdido demasiado el tiempo en preparar esta ponencia en tonterías y he mirado la que más conozco que es la de desarrollo económico y competitividad de la última del diecinueve he mirado las enmiendas qué he visto

el programa de innovación y estrategia de competitividad salvo que masacran en el capítulo segundo no hay ninguna enmienda ni de incremento ni de nada en el de investigación agraria el grupo popular

a los centros azti y neiker en el programa de tecnología bildu reduce en quince millónes de euros y en el de desarrollo industrial y apoyo a emprendedores cien millónes de euros para dedicarlo a

es loable avanzar en esas materias pero tuvieron que echar mano

es decir reducían esos programas eso hace solo un año

dormía en el baúl de los recuerdos ahora un año después la sacan otra vez para pedirle al gobierno que gaste ochocientos millónes de euros más se dan cuenta que una cosa es predicar y otra es dar trigo

son ustedes mucho quizás demasiado pero para dar trigo

de las del señor arriola en el que puede ver disposición de gasto en blanco obligaciones en blanco pagos en blanco ahora no dudo

de que a treinta y uno de diciembre por supuesto que van a ejecutar

ahora también le tengo que decir a ver si a nosotros ya nos ha quedado claro

los objetivos que teníamos hace cuatro años son inviables si por eso no hemos aprobado lo que probamos hace cuatro años que es lo que nos presenta este grupo que ustedes aprobaron y ustedes aprobaron ya sabemos que económicamente es inviable no nos lo repita pero claro es inviable después de tres años de esos gobiernos lo que para todos era viable hace cuatro años

que nos vamos a abstener porque ya es inviable porque ese acuerdo al que llegamos hace cuatro años es inviable económicamente no tiene sentido seguir repitiéndolo

el cinco por ciento del presupuesto no implica que el gasto sea el cinco por ciento más cada año porque si la ejecución del presupuesto no va por ahí

y yo le reconozco una capacidad empezando por el señor consejero

infinita se la reconozco porque son muy capaces todo el gobierno incluido el lehendakari

ahora me parece un poco lamentable que usted nos diga que en la ejecución estamos en prórroga como estamos en prórroga no se ha podido incrementar las partidas algunas las han bajado en la prórroga no se han podido incrementar las partidas pero es que las prioridades de este gobierno en la prórroga ninguno era de inversión

ni una coma de las leyes de modificación de la prórroga sueldos públicos dependientes de la administración no tuvo ningún empacho en decir

a los grupos de la oposición que no hemos planteado eso porque eran de lectura única se lo recuerdo ni si quiera podíamos plantear enmiendas

que nos hizo este gobierno por lo tanto no nos haga trampas en el solitario y señor tellería yo ya sé que

el treinta y uno de diciembre es la fecha clave en la cual se ejecutan casi todos los presupuestos

también nos gustaría a los humildes parlamentarios de esta cámara señor azpiazu

digo por poder saber si efectivamente el treinta y uno de diciembre del dieciocho se ejecutó todo lo que dicen ustedes que va a ocurrir en el treinta y uno de diciembre del diecinueve pero es que

comprobar eso y por cierto habla usted de enmiendas pues usted sabe

dos presupuestos que pactamos con este gobierno la mayoría del dinero de nuestras enmiendas era a incrementar las inversiones

pero de momento lo que comprobamos es que en los nueve meses que han transcurrido hay partidas que

unilateralmente estando prorrogadas y otras

enseño otra vez del departamento cero cero en todo

le reconozco al señor arriola su infinita capacidad en los últimos meses es como el sprint final de ejecutar el presupuesto sobre todo el de inversiones

al cien por ciento y yo repito que yo creo que

en que un objetivo era viable y cuatro años después

ya es inviable hombre algo habría que reflexionar eskerrik asko

la iniciativa y la iniciativa final transaccionada con el grupo eh bildu al que

agradeciendo la disposición que han tenido a llegar a un acuerdo

no así en cambio los grupos que sostienen al gobierno donde en mi opinión no ha habido ninguna voluntad de intentar tan siquiera explorar la posibilidad del acuerdo esta iniciativa

sobre todo el planteamiento que traemos a debate tiene como objetivo mejorar las políticas y las actuaciones de la administración pública destinadas a garantizar el respeto por los derechos que asisten a las y los trabajadores en nuestra comunidad creo que nadie discutirá y nadie va a discutir que a trabajadoras y trabajadores les asisten determinados

que son violentados de manera cotidiana diría yo a pesar de las herramientas existentes para evitarlos desde el más elemental derecho a la vida

violentado pasando por el derecho a tener unas condiciones laborales dignas el cumplimiento por lo recogido en los convenios colectivos

y otros una de las consecuencias que nos ha dejado la última crisis económica como resultado de ella misma pero no solo

es la precarización de las condiciones laborales una precarización cuya cristalización no solo tiene que ver con la nueva legislación existente que tanto

no solo tiene que ver con los tipos de contratos no solo tiene que ver con la parcialidad involuntaria etcétera es decir no solo tiene que ver con las condiciones formales de los empleos sino que tiene que ver también con las condiciones reales

condiciones materiales en las que se trabaja en las empresas de nuestro país son dos cuestiones a abordar las condiciones formales y las condiciones

sobre la que el gobierno vasco puede y debe actuar con determinación como máximo responsable de que se respeten los derechos de las y los trabajadores aunque también es evidente en nuestra opinión que la actitud del propio lehendakari respecto a los representantes de las y los trabajadores no invita

en sus políticas para garantizar estos derechos me refiero de manera específica a las últimas declaraciones conocidas del señor lehendakari respecto a la huelga del metal sobre la que tendré oportunidad de preguntarle

y por eso pensamos y por eso planteamos esta iniciativa pensamos que el gobierno vasco no tiene una política para garantizar el respeto de los derechos laborales esto no quiere decir que el gobierno vasco no haga nada me gustaría aclarar esto también no décimos eso pero sí décimos que no hay una política diseñada para garantizar adecuadamente el respeto a los derechos de las y los trabajadores la inspección de trabajo hace su tarea

y la profesionalidad de sus profesionales no está en cuestión creo que saben ustedes que mi grupo parlamentario no ha cuestionado la profesionalidad

se lo hemos trasladado también a la propia consejera de trabajo en alguna ocasión pero la plantilla de inspectores y subinspectores ronda

con este debate y con otros estamos hablando de una dimensión absolutamente insuficiente para atender una realidad de cientos de miles de puestos de trabajo y de miles de empresas en euskadi aumentar los recursos en inspección de trabajo es algo que nosotros defendemos y que incluimos también

digo esto último para aclarar que nuestro planteamiento es para buscar nuevas medidas de refuerzo para que la lucha contra los abusos y las violaciones de los derechos de los trabajadores sea eficaz y llegue a una realidad a la que ahora solo se llega superficialmente

sustituir el papel que debe jugar la inspección de trabajo tal y como interpretaron algunos grupos cuando trajimos una iniciativa muy similar a esta

al contrario es un planteamiento para buscar medidas que puedan reforzar la propia labor de la inspección de trabajo y para comprometer también a nuestra administración de una manera integral en la defensa de los derechos de las y los trabajadores yo espero que los grupos que no van a respaldar nuestra iniciativa de manera especial los grupos que sostienen al gobierno

porque creo que es una interpretación intencionada o malintencionada creo que ustedes saben perfectamente lo que buscamos con estas propuestas más allá de que las compartan o no me gustaría añadir también porque creo que es importante que la iniciativa

modula nuestro planteamiento inicial lo modula con la intención de buscar apoyos lo modula con la intención de encontrar acuerdos

no están de acuerdo con la misma no es grave que no estén de acuerdo con nuestros planteamientos ni siquiera es grave que no estén de acuerdo con nuestros planteamientos modulados lo que sí me parece algo más grave es que no se haya hecho ningún esfuerzo para intentar acordar nada este gobierno muchas veces

de la necesidad de la capacidad de acuerdo y creo que en esta ocasión desde luego por parte de los grupos que sostienen al gobierno esta ha sido nula me preocupa sin embargo aún más no solo que nuestra iniciativa no vaya a salir adelante

ha sido la de decir que en materia de control de las condiciones laborales las cosas

eso es lo que dice y lo que se desprende de la enmienda a la totalidad planteada por el partido socialista de euskadi y por el partido nacionalista vasco una enmienda totalmente autocomplaciente con lo que se está haciendo una enmienda que no aporta nada nuevo que no propone

en esta materia y que proponemos en nuestra iniciativa para que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi consideren que no se debe apoyar

proponemos en primer lugar la elaboración de un protocolo de colaboración entre las diferentes administraciones en materia de condiciones de trabajo y cumplimiento de la normativa laboral normalizar y protocolizar la colaboración que diferentes administraciones

en colaboración con las centrales sindicales para garantizar que se respeten los derechos laborales esta medida no es contraria a la ley esta medida

está prevista de hecho en la ley y supondría en nuestra opinión una herramienta más que útil a la hora de abordar con eficacia la defensa de los derechos de las y los trabajadores

o el gobierno cree que ya existe esa coordinación y es eficaz

ni protocolizarla ni darle ningún tipo de vuelta a la misma me gustaría preguntar también de qué manera esta medida sustituye la labor de la inspección de trabajo creo que es algo que ustedes sostienen o al menos sostuvieron en el anterior debate

de ninguna manera no lo hace al contrario puede suponer una fuente de información a la propia inspección y puede suponer sin duda una expansión de la cultura de la prevención en la que tanto se insiste y que nosotros compartimos

en segundo lugar proponemos que se estudien dos cuestiones relacionadas entre sí la colaboración directa mediante un protocolo específico entre inspección de trabajo y el departamento de seguridad

para la investigación de los delitos contra los derechos de las y los trabajadores nosotros estamos convencidos de que son medidas contundentes en la defensa

tiene unidades específicas para determinados tipos de delitos por qué no va a tener una unidad especializada en los delitos contra los derechos de las y los trabajadores estos derechos

son menos graves los delitos contra los derechos de las y los trabajadores que otro tipo de delitos para nosotros desde luego que no y por lo tanto nos parece que es una medida que como mínimo debería ser tomada en consideración y que creemos

modulada como decía lo que estamos pidiendo es que se estudie esta posibilidad

en las huelgas y actúa y no actúa sin embargo en defensa del derecho de huelga por poner un ejemplo y esa es una realidad indiscutible y es que la violación del derecho de huelga no es un delito lo es y este solo es un ejemplo de por qué podría ser útil esta cuestión

actúan e investigan cuando se han cometido determinados delitos contra los derechos de los trabajadores y por lo tanto

sería útil y permitiría no solo actuar cuando se han cometido sino que permitiría además prevenirlos e investigarlos con mayor eficacia nosotros estamos

aun así nosotros hemos modulado como decía nuestra propuesta inicial porque nosotros ya marcamos nuestra posición isiltasuna

esta iniciativa o una iniciativa muy similar y lo que pretendíamos ahora

y que se avanzase nos hemos encontrado la verdad con un muro bastante grueso

nada a cerca de nuestra iniciativa y por el contrario nos encontramos con una enmienda del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi que como decía

de control y de respeto a las condiciones laborales de respeto a los derechos de las y los trabajadores se están haciendo las cosas muy bien

es lo que más me preocupa de todo más allá del resultado de la votación me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo porque yo estoy absolutamente convencidísimo de que hoy mismo en euskadi hay cientos de trabajadoras y trabajadores que se han visto

en mayor o menor medida y que saben que no van a poder hacer nada al respecto por diferentes cuestiones una de ellas es el miedo al despido y me preocupa que el mensaje que salga hoy de aquí es que no se preocupen que esto está

hoy están haciendo labores por encima de su categoría

reciban el mensaje de que esto está perfectamente controlado me preocupa que quienes hoy están levantando pesos que no se pueden levantar en sus tajos

me preocupan estas cuestiones por eso me hubiera gustado que hablásemos dialogásemos y negociásemos y nos hemos encontrado con un muro a pesar de nuestra iniciativa modulada nosotros pensamos que nuestros objetivos nuestras intenciones y nuestras propuestas son serias y serían estamos dispuestos a hablar con los partidos que sustentan al gobierno pero pensamos que no han hecho ningún esfuerzo y nos preocupa que esto sea el reflejo de este mensaje que yo he venido lanzando al lehendakari no solo antes sino también en el pleno de política general nos preocupa que esto sea el reflejo de un gobierno que no mira por los intereses de las y los trabajadores

sí gracias presidenta debatimos hoy

al control de las condiciones de trabajo y el cumplimiento de la normativa laboral

a otra iniciativa suya que se debatió en este pleno el once de octubre del dos mil dieciocho hace ahora un año y es idéntica porque no ha cambiado nada ni la justificación ni lo que se proponía por ustedes en la proposición de ley

haciendo referencia a la elaboración de un estudio en el último segundo en la transacción pero la enmienda y la iniciativa es exactamente la misma

usted no convenció con sus argumentaciones a ninguno de los grupos de esta cámara y se aprobó

con el voto a favor del partido popular que no presentó enmienda a esa iniciativa porque era la única que centraba el tema

diciendo que si había que afinar la iniciativa ustedes estaban dispuestos a hablar

y de nuevo a reproducido su iniciativa sin cambiar prácticamente nada lo que estaba en un párrafo lo pone en dos

un juego de cintura de último segundo pero es completamente igual y ahí la mayoría

las argumentaciones por qué no veíamos esa iniciativa lo que no entiendo es que el grupo eh bildu le dijera entonces y argumentara que no se podía hacer lo que ahora ha firmado y en esta iniciativa ha cambiado un poco el decir bueno vamos a decir

pero argumentaba que los ayuntamientos no podían asumir todo eso etcétera etcétera

que sí se puede que se estudie y que a ver si se puede hacer usted señor hernández y señora otamendi usted ahora con la enmienda transaccional que ha firmado

ayuntamientos de recursos para que puedan colaborar en el control de las condiciones de trabajo reconocen incluso en la iniciativa que aunque no hay medios en los ayuntamientos para ello pues que asuman más competencias y aunque no tengan formación pues que ayuden a la inspección de trabajo a realizar esas funciones yo les pregunto eso mejora la eficacia de las actuaciones que se realizan en este momento yo creo que no y además que colaboren con policías locales

y que creen unidades especializadas en la ertzaintza y todo ello

es decir usted lo que quiere es cambiar competencias no por ley sino a través de protocolos de actuación y evidentemente estábamos en desacuerdo

primera vez que trajo aquí esta iniciativa y estamos en desacuerdo hoy también y sigue sin entender que tiene que

se tiene asignadas por ley en tanto en cuanto no se acuerde ese traspaso de competencias según usted no entiende por qué se negocia o acuerdan traspasos de competencias entre administraciones diferentes si se puede firmar un protocolo

de unos a otros cuando nos venga en gana pues oye hablamos de condiciones de trabajo hablamos de prevención de riesgos laborales

y a través de un protocolo podemos cambiar lo que nos dé absolutamente

pueden asumir estas competencias yo creo que no y tampoco la tienen no se pueden mezclar las competencias de la inspección de trabajo

no se puede tratar de reforzar las actuaciones de la inspección de trabajo

con competencias distintas y confunde los hechos que constituyen una infracción administrativa y una infracción penal cuya investigación y sanción son completamente diferentes en mi intervención del once de octubre del año pasado indiqué

pero que manifesté nuestro total desacuerdo con las medidas que proponía entonces y que vuelve a repetir exactamente igual ahora nosotros tenemos buena intención en nuestras argumentaciones por supuesto que sí y además creo que son las correctas

y que no estamos equivocados y el que está equivocado precisamente en esta iniciativa son ustedes sabemos que

no es la vía estamos de acuerdo que en los últimos años se ha producido un incremento de la precarización de las condiciones de trabajo derivadas de reformas

sobre horas realizadas en los contratos a tiempo parcial etcétera etcétera también

un control pero a través de la inspección de trabajo tanto en materia laboral como en materia de seguridad y salud laboral

porque es la que tiene asignadas esas funciones de vigilancia y control en la ley veintitrés barra dos mil quince de la ley ordenadora de la inspección

y se lo dijimos el grupo socialista el grupo nacionalista vasco y el grupo popular el once de octubre del dos mil dieciocho solo ha cambiado una cosa en la propuesta actual

entonces hacía referencia a la necesidad de una formación específica en materia de control de las condiciones laborales que ahora quita en la iniciativa actual y eso no sé si se debe a que ya no le da importancia a esa formación o no puede

el once de octubre que no me pudo responder en el turno

qué creía usted suficiente en la formación que se le tenía que dar o cuánto tiempo era suficiente para esa policía local y

le pregunté si sabía cuánto tiempo podía tardar un inspector de trabajo normalmente

a cuatro años lo que hubiera tardado en sacarse una legislatura

no supo decirme en la réplica cuánto tiempo podía ser suficiente a esa formación y claro ahora ha quitado la necesidad de esa formación en su iniciativa por no tener

no sabe cómo contestar contento tiene usted a los opositores de inspección de trabajo que dedican años de su vida y formación

a formarse y para poder aprobar esas oposiciones

o con una formación pequeñita puede cualquier profesional pues ejercer las funciones y poder mirar temas de prevención de riesgos laborales material laboral en materia de condiciones de trabajo etcétera eso lo que demuestra es que no conoce cuánto tiempo se dedican a formarse estos profesionales

se debe de seguir dedicando a lo que se tiene que dedicar que es al control de delitos y luego se efectuarán las actuaciones necesarias entre la inspección de trabajo la tesorería general de la seguridad social

como se sigue efectuando en este momento

también le quería indicar que cada cuerpo debe realizar bien sus funciones las funciones que tiene encomendadas

para incrementar las actuaciones de la inspección de trabajo además no solamente hace falta aumentar el número de efectivos se puede conseguir mayores resultados con ello también se puede conseguir con otra medida mejorando el uso de las herramientas que tiene a su disposición por eso se pusieron en marcha campañas en el país vasco por parte del departamento de trabajo y justicia a través de la inspección de trabajo en el control del fraude de ley y la economía irregular en el dos mil diecisiete se revisaron doce mil quinientos cuarenta contratos

en fijos y a tiempo completo en el dos mil dieciocho diecisiete mil novecientos ochenta y nueve contratos con seis mil quinientos doce transformados en indefinidos

en la campaña estatal que se inició en agosto de dos mil dieciocho

y se han convertido en indefinidos o a tiempo completo cinco mil cuatrocientos treinta en total en toda la legislatura se han revisado cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno y se han convertido quince mil doscientos setenta con lo cual

más pero sí decir que evidentemente el incremento tan exponencial de los resultados obtenidos en las actuaciones de la inspección de trabajo se ha conseguido con un pequeño incremento de la plantilla pero se ha conseguido ese incremento tan exponencial

para detectar posibles incumplimientos en las contrataciones en las empresas es por ello por lo que vamos a volver a votar a favor de la enmienda a la totalidad conjunta presentada por el grupo nacionalista vasco socialista y espero que en esta ocasión la vuelva otra vez a apoyar el grupo popular porque es la única que va en el camino que hay que seguir y no buscar soluciones que no sirven para nada y sobre todo que son contrarias

konprometitzen gara señor hernández para nosotros es esencial que la administración laboral despliegue todo su potencial

facilitador de la correcta aplicación de las condiciones de trabajo mediante el ejercicio de las funciones inspectoras y consultoras y mostrando

laboral nos sitúa su iniciativa en el control de las condiciones de trabajo y el cumplimiento de la normativa laboral

no se le escapaba que íbamos a decirle que esta iniciativa es similar a otra que presentó el pasado año de hecho cuando la leí inicialmente y es cierto

y cuando recuperé la anterior las puse en paralelo tuve la sensación de encontrarme

muy popular en otros tiempos las diez diferencias dos fotos dos dibujos similares con concretas diferencias que hay que encontrar y me fue difícil encontrar las diferencias párrafos enteros idénticos

una fecha que es bastante curioso le da por presentar esta iniciativa en una

la parte propositiva cuatro divididas antes eran dos ahora son las dos mismas pero divididas en cuatro

hoy dice una de las líneas de trabajo es el pasado año decía una de las líneas de trabajo podría ser

porque me parecía que le faltaba a usted actitud y que se materializaba en

y le decía yo qué quiere que vayamos probando en algo que podría ser veo que ha corregido este detalle estupendo

pero el dibujo la foto es esencialmente la misma por mucho que ahora nos venga a decir y de aquella iniciativa salió un acuerdo salió un acuerdo basado en nuestra enmienda a la totalidad como ha comentado la señora sánchez y el gobierno está cumpliendo eficientemente eficazmente ese acuerdo aun así a pesar de

entiendo que usted está en su derecho de plantear de nuevo esta cuestión y lo respeto profundamente yo lo tendré que defender y quiero que sepa que me puse a ello como le he dicho con todo mi interés y de un análisis inicial de los planteamientos básicos

detectamos esa preocupación en la ciudadanía es una preocupación compartida

una preocupación con dos dimensiones la cuantitativa y la cualitativa en forma de objetivo nosotros también lo tenemos incrementar el empleo es decir reducir el desempleo

la calidad del empleo esta iniciativa que hoy nos trae está más centrada como le dije en su día en ese segundo objetivo compartimos también

que es deber de las instituciones diseñar las soluciones desplegando todo su potencial para mejorar estas situaciones compartimos la necesidad de impulso institucional

en su justificación de plantear iniciativas que lleven a conseguir la mejora sustancial de las condiciones de trabajo nosotros lo tenemos claro y en este sentido recogemos o recogimos en nuestro programa electoral ciento setenta y ocho compromisos cincuenta y seis de ellos

de ellos seis concretos compromisos en el ámbito del debate de hoy seis compromisos concretos en este ámbito de debate y que se despliegan en once iniciativas y cuarenta y ocho concretas actuaciones

y que están recogidas en el programa de gobierno como no podría ser de otra manera en un firme compromiso de trabajar conjuntamente con los agentes sociales para mejorar las condiciones del trabajo en este sentido el gobierno entiende que la inspección de trabajo es una herramienta fundamental

como ya saben nosotros hemos enmendado a la totalidad esta proposición no de ley que no le ha sorprendido nuestra enmienda y lo hemos hecho fundamentalmente

en segundo lugar por una razón conceptual y que para mí es mucho más importante y es que más allá de la razón normativa más allá de venir recogida en una ley

y la administración pública tiene la obligación de optimizar la utilización de estas herramientas para dar respuesta a las necesidades y a los problemas con los que se enfrenta una sociedad

que quiere tener ese apellido tiene que progresar sistemáticamente en la utilización de herramientas cada vez

y que den entrada a la especialización deben perseguir objetivos de mejora constante en eficacia y en eficiencia yo señor hernández creo que sigue sin ser consciente del impacto real que su propuesta produciría

y nos dice no no si solo es estudiar ya ya nos dice

solo es estudiar pero luego cuando se pone aquí a decir ejemplos yo le veo que no es solo estudiar veo que ya lo está poniendo en marcha por lo menos en su mente

funciones de órganos policiales hacia áreas para las que no están especializados en lugar de potenciar desde la racionalidad la colaboración entre servidores públicos

la especialización y en el párrafo sexto

dice en otros países de nuestro entorno a mí sinceramente

me gustaría si usted pudiese que me ampliase esta cuestión

entre la inflación administrativa versus la inflación penal me gustaría que desarrollase este concepto del derecho comparado me interesa mucho es que no lo conozco no conozco esos esquemas no sé dónde se produce señor hernández y yo le pregunto

es conocedor de la realidad de las policías locales en euskadi especialmente en los municipios más pequeños también se lo pregunté anteriormente

donde los recursos existentes agotan sus posibilidades en el cumplimiento de las competencias que le son propias

dos personas policías municipales en muchos municipios de nuestro país además de

que son consecuencia del empleo sistemático por parte de este gobierno de las cada vez más sofisticadas herramientas a las que me refería antes me preocupa me preocupa que se minimice eso la señora sánchez ha hablado de ellos

en menos de tres años menudo trabajo

señor hernández a su propuesta en cuatro puntos hemos enmendado a la totalidad proponiendo por un lado que a través de la inspección de trabajo y de seguridad social única competente para la vigilancia del control y las condiciones laborales

continúe actualizando esas precisas herramientas reforzando los servicios de inspección laboral yo le diría usted dice que avanza mucho no sé igual esto debería comentarlo lo del avance con el señor casanova lo de la tortuga y esas cosas yo veo más bien un avance corto

en el texto en el texto transado respecto al pasado año porque en el texto original cero avance

solo podemos tener una posición mantener nuestra enmienda y así lo haremos eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

inevitablemente me voy a repetir y me voy a repetir por varias razones en primer lugar porque intervenir la última

conlleva esto que muchas de las cuestiones que yo voy a exponer aquí

pues ha sido más acorde porque hace un año prácticamente un año se presentó una proposición que es prácticamente igual

sin querer frivolizar pero igual que el almendro vuelve a casa por navidad pues parece que por estas fechas siempre

el año pasado la presentaron ustedes a finales de agosto este año lo han presentado a principios de septiembre y en octubre se ha debatido

si uno compara algunos párrafos son literales cambiados igual el orden pero hay otros que son literales exactamente igual y entiéndame yo no tengo ningún problema en volver a debatir todas las veces que haga falta sobre el cumplimiento de la legislación laboral

sobre la mesa medidas para acabar con la siniestralidad laboral pero indefectiblemente ante una iniciativa igual pues por parte de este grupo tenemos que señalar lo mismo y la verdad es que y dada la hora de la tarde que es pues podría decir me remito a lo que dije

entre lo que me gusta hablar y que me parece una falta de respeto no en esta iniciativa sobre todo una falta de respeto al proponente pues voy a exponer pero me va a permitir que me repita en muchas de las cuestiones en el objetivo

que usted propone con esta iniciativa estamos de acuerdo no solamente el grupo popular yo creo que estamos de acuerdo todos los grupos que es como le decía poner todos los medios para luchar contra la precariedad laboral contra la siniestralidad laboral y se han puesto encima de la mesa en muchas ocasiones y se ha sometido a debate en muchas ocasiones en esta cámara y se ha acordado también muchas iniciativa al respecto porque como le digo la voluntad es común a todos los grupos

estamos de acuerdo con lo expuesto en la iniciativa y con lo que usted ha dicho hoy aquí de esa preocupación

de no precariedad y por la siniestralidad laboral lo dije entonces y se lo voy a repetir ahora claro que hay ámbito de mejora claro que hay ámbito de mejora

accidente laboral que los accidentes no pueden ser consustanciales al puesto de trabajo y que no se pueden permitir el incumplimiento de la normativa laboral y de las condiciones de trabajo

como le digo hay ámbito de mejora y yo además usted

zurrarle hablando de modo coloquial al gobierno pero también hay que decir que puede que se puedan hacer más cosas

que es muy preocupado por estos temas ha visto estas actuaciones del primer semestre de dos mil diecinueve que se están haciendo

qué es necesario implementarlas medidas pues seguramente pero que hay que reconocer también que se va avanzando y que se van poniendo los medios para que esa bueno pues para mejorar en la inspección

es que hay que reconocerlo todos como le repito en ese objetivo estamos de acuerdo todos en impulsar empleos de calidad en que se exijan medidas de seguridad en denunciar desde todas las instituciones desde todos los ámbitos el incumplimiento laboral en poner todos los medios en frenar esa siniestralidad laboral y por ello

creemos necesario y lo hemos acordado en muchas

y la vigilancia de los cumplimientos pero cómo se lleva a cabo eso ahí es donde discrepamos porque usted aunque en su iniciativa original lo haya dividido y en la

el objetivo que subyace en el fondo es el mismo que hace un año es el mismo que hace un año y es cómo se lleva a cabo la inspección porque ustedes han puesto la fórmula de

pero esa coordinación existe esa coordinación existe y en el fondo lo que ustedes quieren lo que subyace en su iniciativa claramente lo pone usted

agentes policiales para llevar a cabo labores de vigilancia en materia de condiciones y cumplimiento de normativa laboral ese es el objetivo de la iniciativa por mucho que luego lo hayan desarrollado en distintos puntos y le hayan dado la forma de la colaboración

lo que en el fondo quieren es que la inspección del cumplimiento de la normativa laboral no recaiga exclusivamente en la inspección de trabajo sino que haya policías i sea ertzaintza e incluso policías locales

y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones y aquí hubo una iniciativa hace dos años y nosotros la apoyamos para reforzar la plantilla y los medios materiales

sí pero aunque deba incrementarse esa plantilla

la labor de inspección debe recaer en los inspectores de trabajo y no

ni en la policía local y por varias razones y una de ellas en primer lugar el que se creara una unidad

al margen de las complejidades a las que luego me referiré supone un aumento de la plantilla de policía todos los grupos que están aquí

en que aumente la plantilla de la ertzaintza cuando continuamente están diciendo que hay excesivamente muchos policías en euskadi muchos

pero además es que se lo han dicho aquí yo también se lo dije la inspección laboral requiere una especialización que no es una tarea sencilla ni es una tarea rápida abarcar toda la extensa y compleja normativa laboral requiere muchísimo tiempo mucho tiempo pero

la fiscalía en muchos casos hace referencia en sus memorias a la complejidad de los delitos laborales y exige la especialización de los fiscales

desde luego paralela pero no tan especializada como la de los inspectores de trabajo requiere una especialización posterior y usted pretende que esa especialización

que requiere a la fiscalía la tengan pues no sé si con un curso se no sé cuántos

y los policías locales pero es que además independientemente de la complejidad y de la especialización

no nos podíamos entrar a hacer disquisiciones entre ilícitos administrativo e ilícitos penales pero es que hay que hacerlos es que hay que hacerlos señor hernández porque no es lo mismo

en absoluto cuando estamos hablando del incumplimiento de las condiciones laborales

cuya persecución e investigación le corresponde a los inspectores de trabajo y cuando estamos hablando de incumplimientos y de ilícitos penales eso es lo que les corresponde a la ertzaintza como policía judicial dentro del ámbito judicial porque una cosa es perseguir la precariedad laboral la siniestralidad laboral el incumplimiento de la normativa laboral y otra pues por ejemplo la persecución de la explotación laboral que supondría la comisión de un delito de los derechos de los trabajadores delitos que están recogidos en el titulo quince del libro dos

y evidentemente cuando se produzcan estas conductas delictivas pues ahí tendrá que intervenir la justicia y como le digo la ertzaintza como policía laboral pero desde luego no para contraer el cumplimiento de las condiciones laborales se lo dije en ese momento y se lo vuelvo a decir ahora usted

revisando su declaración de la renta o la mía para ver si hemos cumplido la legislación fiscal

no existe un cuerpo específico que es el de los inspectores de hacienda que se encargan de esas cuestiones y cuando existen delitos fiscales

como policía judicial porque es que hay que distinguir entre los inspectores de hacienda los agentes tributarios los inspectores de trabajo cada uno tiene un campo de actuación

protocolos porque ya existen actuaciones conjuntamente actuaciones conjuntamente cuando en una inspección de un inspector de trabajo valga la redundancia o en una inspección fiscal se ve conato de acciones delictivas inmediatamente inmediatamente

pasa a otro orden de actuación pero como le digo el que todos tengamos que poner

para acabar con la precariedad laboral y para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral no quiere decir que todos tengan que hacer de todo

aquello para lo que están especializados y para los que están

bien creo que ustedes sobre todo la señora sánchez también el señor aiartza y también la señora llanos insisten en una cuestión

nuestra iniciativa no dice eso nosotros no estamos proponiendo cambiar las competencias de nadie

que se atengan a los textos tanto al de la iniciativa original como al de la transacción alcanzada con eh bildu para saber

proponiendo que determinadas instituciones asuman competencias que no tienen coordinación entre

de trabajo tanto en la iniciativa original

como en la transacción en qué punto aquí hay un cambio de competencias

es entrar en sus competencias es que acaso nadie colabora con inspección de trabajo es que cuando actualmente se colabora con inspección de trabajo que ustedes mismos han dicho que se colabora

no entonces qué estamos proponiendo un protocolo sí

porque pensamos que de esta manera va a ser más eficaz va a ser más eficiente y esta es una de las cosas que ha cambiado con la iniciativa

que es cierto que en el fondo es la misma iniciativa claro e insisto en ella pero también es cierto que como dije en aquella ocasión hemos venido con ella

ni en la iniciativa original que hemos presentado en esta ocasión ni en la transacción con eh bildu que además tenía

con esta cuestión no señor aiartza

habla de ayuntamientos sí habla de que los ayuntamientos colaboren con la inspección de trabajo y que esto se haga a través de ese protocolo claro que sí

y dígame en qué parte de este texto dice que la policía municipal de determinado municipio vaya a hacer las labores de inspección de trabajo esto no es real esto se lo están inventando ustedes

ni en la transaccionada y ustedes mismos están diciendo que se colabora actualmente con inspección de trabajo y lo que décimos aquí es que esto se protocolice porque pensamos que eso hará

y pueden ustedes insistir en que mis intenciones ocultas son las de jorobar a los inspectores de trabajo y sustituir sus competencias no de eso

creo que tanto en la iniciativa que hemos presentado esta vez la diferencia luego con la transacción es que se estudie y en la iniciativa original

de crear esa unidad la unidad es para investigar los delitos afinamos bien

ya investiga delitos contra los derechos de las y los trabajadores e igual que he dicho antes

se puede compartir o no pero no se puede presentar como que se está proponiendo algo irrealizable o algo que trasgrede la legalidad

existen las unidades especializadas para otro tipo de delitos por qué este no los delitos contra los derechos de las y los trabajadores son

importantísimos por qué no y finalmente además solo estábamos pidiendo como ha dicho la señora otamendi que se estudie ni tan siquiera ustedes están

de esa cuestión y creo que sí le respondí señora sánchez

no soy yo quien va a determinar la formación

los agentes que estén en esa unidad especializada no soy yo quien vaya a determinar la formación que deban tener funcionarios de diferentes administraciones que vayan a colaborar a través de su trabajo cotidiano con la inspección de trabajo

el papel fundamental a la hora de definir cuál es la formación adecuada es que cuando se crea una unidad

los delitos contra el medio ambiente no se determina qué formación tienen que tener esos agentes digo yo que se estudiará cuál es la formación concreta que deben de tener creo que queda claro que nuestra iniciativa es buena creo que queda claro que no hay ninguna intención de cambiar competencias creo que nuestro único objetivo más allá del objetivo que pueden decir que compartan

contra la explotación laboral el objetivo es claro mejorar la coordinación y la colaboración entre las diferentes instituciones que tenemos y eso no es ningún cambio competencial creo que esto queda bastante claro y que no hay argumentos para decir que lo que digo es una invasión competencial de la inspección de trabajo si nos

no hay nada para decir que proponemos invadir las competencias de la inspección de trabajo absolutamente nada otra cosa es que ustedes crean que yo tengo intereses ocultos pues en hacer esto que es muy legítimo yo les puedo decir que no no les voy a convencer ustedes

nosotros hablamos e intentamos dialogar y nos esforzamos en llegar acuerdos cuando consideremos

la pena intentar llegar a un acuerdo pero en esta iniciativa ni consideramos el once de octubre del dos mil dieciocho

hoy diez de octubre del dos mil diecinueve que se tenía que hacer ningún esfuerzo en tener que llegar a un acuerdo porque no consideramos que esta iniciativa es acertada y tenemos nuestro perfecto derecho de pensar eso

sino de quién tenía y quién tiene las competencias para ello y quién debe de seguir realizando esas funciones para conseguir la mayor

correspondientes y en mi intervención le he explicado todos los argumentos que consideramos que son suficientes para rechazar la iniciativa

transaccional han intentado para poder llegar a un acuerdo suavizar algo o cambiar algo como le he dicho hacer un giro de cintura en el último segundo para ver si se podía

iniciativa absolutamente idéntica a la de hoy que usted defendió el once de octubre que no apoyaba esa iniciativa y hoy ha hecho un giro con la misma iniciativa y ha llegado a una enmienda transaccional y usted ha intentado justificar ese giro de cintura que ha hecho

como ha podido pero la realidad es que es la misma iniciativa que entonces y aunque ahora hablen de un estudio es que no consideramos que tenga que realizarse

las actuaciones de control de las condiciones de trabajo y del cumplimiento de la normativa laboral sino que el que lo tiene que realizar es el que lo está realizando ahora que es la inspección de trabajo y seguridad social y por cierto fíjese si me he leído su

que les voy a corregir una cosa que han puesto en el punto cuarto porque ustedes hablan de subinspectores o subinspectoras de trabajo y eso no existe existen subinspectores de empleo y subinspectores de seguridad y salud laboral pero no existen subinspectores o subinspectoras de trabajo o sea que fíjese me leo lo que pone la enmienda transaccional que deberían de haber corregido porque no existe no estamos de acuerdo con ella por eso he dicho que vamos a defender la enmienda a la totalidad que presentamos en su día el partido nacionalista vasco y el partido socialista porque es la única

hablamos dentro de la misma de la necesidad de seguir incrementando y reforzando con más recursos humanos la inspección de trabajo pero también le he dicho en mi primera intervención

que es suficiente para conseguir mejores resultados y lo hemos demostrado con los datos que le he dicho en mi primera intervención utilizando mucho mejor las herramientas que se tienen y cruzando mejor los datos se ha conseguido un resultado exponencialmente muchísimo mayor al que se venía consiguiendo en años anteriores y le he dicho las cifras casi cincuenta mil contratos revisados

en contratos indefinidos o a tiempo completo los datos cantan por sí mismos y por otro lado dicen bueno que se haga un estudio pero es que nosotros creemos señor hernández

realizar esas actuaciones por la policía local o por la ertzaintza

en caso de huelga pues sería importante que actuaran hombre en caso de huelga yo me imagino que usted lo que quiere es que se vean si hay sustituciones o no de los trabajadores en huelga

y además es que le entra el inspector de guardia porque tiene prioridad y tiene que ir el que está de guardia ese día y va inmediata y automáticamente y lo realiza y

sustituciones de los trabajadores en huelga realizan las actuaciones correspondientes entonces qué añadiría más

o un profesional que no tiene la presunción de certeza y que no valga para nada luego en la actuación que realiza la inspección de trabajo eso es lo que quiere pues vaya eficiencia en el control

vaya eficiencia nosotros no lo consideramos así tiene que seguir haciéndolo el profesional que tiene las competencias asignadas para ello y además

y seguridad social y en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo serán los subinspectores de seguridad y salud laboral o los subinspectores de

por eso consideramos que nosotros tenemos que defender nuestra enmienda a la totalidad que presentamos y espero

la señora llanos sea de nuevo apoyada y salga nuestra iniciativa
igual que salió el once de octubre de dos mil dieciocho nada más y muchas gracias eskerrik asko

no iba a salir de verdad a los que les he dicho que no iba a salir pero me hace dudar señor hernández me hace dudar y me ha pillado sin gafas además

una aclaración y me decía digo ayuntamientos digo ayuntamientos hombre ya ahora me preocupa mucho más

digo ayuntamientos digo ayuntamientos no digo policías se

que permitan a las policías locales actuar en materia de vigilancia de cumplimiento de normativa laboral y prevención

policías locales dice policías locales policías locales no es su texto en el suyo que era lo que yo decía

tengo que hacer una confesión soy un autocomplaciente

no hay que darle más vueltas soy un autocomplaciente

me creo estas cosas resultados

pero me molesta una cosa que usted lo lanza al gobierno pero detrás de esos cincuenta mil contratos revisados que es

hay un montón de personas la inspección reconózcalo no lo reconoce no dice son ustedes unos autocomplacientes no

dice no hacen ustedes ningún esfuerzo ninguna voluntad hombre

de verdad que lo intento pero no me ponga la zanahoria tan lejos es que lo intento con todas mis fuerzas y se lo he dicho

como el de las policías locales me lo pone tremendamente difícil

tres por tres señora otamendi había

en su enmienda a la totalidad que ha desaparecido y me da pena y

incluye un punto tercero también entonces a mí me llama la atención en la línea de lo que decía la señora llanos

el último ejercicio que ustedes presentaron enmiendas parciales al presupuesto la cuarta parta de sus enmiendas parciales eran de reducción

y ahora nos está planteando aquí la creación de una unidad especializada en la ertzaintza a estudiar ah vale

y para terminar agradecerle señora llanos su apoyo a nuestra enmienda eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderez bertatik con su permiso señora presidenta desde el escaño

no se preocupe señor hernández gobierno pnv partido socialista y autocomplacencia es algo que suele ir

que aunque le ha hecho referencia pero no ha dicho cosa que igual hay que marcar un hito en el calendario si tuviéramos la competencia en euskadi la primera vez que hace una intervención y no reclama una competencia pero en fin

mire señor hernández será eso que no llevaba las gafas y se ha confundido señor hernández tanto en su original en la parte propositiva como ahora muchas cuestiones quedan ambiguas normalmente cuando una cuestión queda ambigua se tiene que interpretar para interpretar la parte propositiva uno a donde tiene que ir es a la justificación

esa ambigüedad queda clara queda clara cuál es el objetivo de su iniciativa y el objetivo de su iniciativa es en el primer punto y de la enmienda transaccional un control adecuado de las condiciones una coordinación para un control adecuado qué quiere decir eso

que hay que hacerlo de otra manera cómo hay que hacerlo que todos hagan de todo

impulsar la colaboración entre la inspección de trabajo y la ertzaintza con objeto de controlar el cumplimiento quién lo tiene que controlar uno u otro

a la justificación qué se deriva de su justificación que los dos lo tienen que hacer lo de la unidad pues estudiar no tenemos ninguna duda que estudiar porque lo del incremento de lo de la policía parafraseando a mi compañero ustedes lo de mucha policía poca diversión lo llevan a todos los ámbitos

es que eso ya lo hemos aprobado en otras condiciones incluso con nuestro voto se aprobó aquí y se ha reforzado y ya le he dicho que si es necesario

no hacía falta esa iniciativa porque su objeto no era este su objeto

se encarguen de la vigilancia de las condiciones de trabajo y nosotros no estamos de acuerdo con ello y esa es la razón por la que vamos a votar en contra de la enmienda de transacción y a favor de la enmienda de totalidad

solución sostenible al conflicto sirio no se puede lograr militarmente asimismo exigimos a turquía que cese la acción militar unilateral

la estabilidad de toda la región exacerbarán el sufrimiento de los civiles y provocarán más desplazamientos nazio batuen erakundeari eskatzen diogu har dezala ekimena egoera honen aurrean